hilabete hauetan zehar durante estos meses lehendakari se ha empeñado usted en la búsqueda de acuerdos que al principio de la legislatura se antojaban imposibles

firmado con las tres diputaciones forales y luego al acuerdo para la reactivación económica y el empleo con el partido socialista primero y el partido popular después

acuerdos que se están viendo concretados estos días con la aprobación del presupuesto de la comunidad autónoma para dos mil catorce han impulsado en este tiempo planes y programas con el objetivo de apuntalar los cimientos del futuro económico de euskadi a través de su apuesta por la economía productiva apoyando bajo el paraguas de la la inversión la innovación

internacionalización planes como el de la financiación del circulante para pymes y autónomos el plan de choque por el empleo el impulso a la internacionalización en el marco de la estrategia basque country

la nueva estrategia de formación profesional todos ellos refuerzan la hoja de ruta económica del gobierno vasco

e impulsar la reactivación de la actividad económica con el objetivo de aprovechar las oportunidades de creación de empleo en este sentido según los últimos datos hechos públicos por lanbide el pasado mes de noviembre el paro registrado en euskadi descendió en tres mil quinientos sesenta y siete personas en la actualidad son ciento setenta y cuatro mil setecientos personas las registradas en lanbide lo que supone

el gobierno vasco ha declarado que este dato positivo se suma a otros indicadores económicos del mismo signo y a pesar de que usted mismo ha insistido en que no hemos salido de la crisis y no debemos caer en autocomplacencias los datos relativos a la recaudación de las haciendas

y de las exportaciones nos llevan a mirar el futuro con cierto optimismo

el año dos mil catorce con mayor confianza los indicadores con que contamos son positivos usted ha citado algunos de ellos yo le citaré ocho de entre todos los que se podrían citar primero y usted ha hecho referencia a ello la estabilidad institucional y presupuestaria este año es probable

que todas las instituciones vascas cuenten con presupuestos aprobados y pactados entre dos o tres partidos políticos segundo usted también ha hecho referencia a ello estamos dejando atrás la recesión todos los indicadores apuntan un leve comienzo del crecimiento

a un crecimiento del producto interior bruto del uno por ciento las cifras de paro no van a seguir creciendo se van a estabilizar incluso a finales del próximo año del dos mil catorce la tasa de paro será ligeramente inferior

crece el sector exterior y las exportaciones en este momento tenemos un crecimiento del cuatro coma cuatro por ciento y todo apunta a que este año euskadi va a batir el record de exportaciones superando los veinte mil millónes de euros

hemos conocido buenas noticias en los sectores de aeronáutica de transporte de energía

vamos a tener también buenas noticias en máquina herramienta y automoción la industria vasca cuenta con buenas expectativas de crecimiento para el año próximo dos mil catorce

solvencia financiera de la administración pública los límites de déficit y de endeudamiento institucional están pactados este año hemos procedido a la consolidación fiscal realizando un gran esfuerzo de rigor presupuestario sexto indicador

los primeros indicadores de cierre de la recaudación del presente año garantizan el cumplimiento de las previsiones de ingresos incluso se podrían superar

iniciamos el año próximo con una reforma fiscal pactada con amplio consenso séptimo el gobierno ha presentado un acuerdo para la reactivación económica que usted mencionaba también

en tres años octavo indicador en el primer semestre del año dos mil catorce van a tener lugar en euskadi dos encuentros económicos de gran relevancia el primero organizado por el ifex en el mes de marzo

de la mano también con el gobierno vasco en la estrategia que tiene en este sentido y el segundo la bienal de la máquina herramienta de junio próximo que se presenta también con buenas perspectivas para el sector las previsiones son positivas tenemos razones para la confianza nahiko arrazoi dugu beraz datorren urteko ekitaldiari

y desde el gobierno consideramos importante que las empresas vascas busquen alianzas tecnológicas alianzas que les permitan como empresas

donde en este momento además de posicionarse necesitan tener dimensión suficiente para hacer frente a sus competidores en los próximos años consideramos importante que tales alianzas se suscriban con empresas de referencia internacional que nos permitan repito estar en una presencia global en un área tecnológica como la de las telecomunicaciones empresas y generando inversiones y en este contexto como euskaltel ha declarado si se están buscando ese tipo de alianzas y creemos que se está haciendo el resultado sería una euskaltel reforzada en ese posicionamiento

más si cabe de lo que ha sido hasta ahora se trata por tanto de desarrollar una actividad tractora en euskadi tanto para el sector de telecomunicaciones como para otros negocios del tejido industrial de euskadi creando nuevas empresas que en este momento no existen

que esta referencia se contemple como base del mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales de las personas beraz zentzu horretatik euskaltelek esan duenez

progenika patricio etxebarria banco guipuzcoano guascor aernnova tabex landata cementos lemona seguros bilbao

en el acuerdo entre el partido socialista y el partido nacionalista vasco dicho documento recoge cuatro acuerdos de país uno de ellos dedicado específicamente a la lucha contra el fraude y al nuevo sistema tributario el segundo de estos aspectos está siendo ultimado estos días en las juntas generales dando curso

sin embargo no tenemos conocimiento hasta la fecha de ninguna iniciativa en torno a la otra gran pata del sistema fiscal más justo solidario y eficiente según lo suscrito

específica constituida por el gobierno y las tres diputaciones forales

se deberá dar cuenta a las juntas generales y a este parlamento para favorecer la colaboración interinstitucional se deben impulsar convenios entre las tres administraciones competentes que deben ser viables en el primer trimestre del dos mil catorce junto con los dispositivos de interconexión informática de las bases de datos

en el acuerdo firmado por partido socialista y partido nacionalista vasco y en lo que los socialistas estamos directamente concernidos a través de las juntas generales la reforma normativa está en este momento a punto de terminar su recorrido en lo que la iniciativa corresponde al gobierno como es impulsar la comisión y la firma de los convenios de colaboración

y añado otro apartado del documento suscrito en septiembre el lehendakari conociendo y compartiendo los objetivos y los contenidos del acuerdo se compromete a desarrollar íntegramente los contenidos del mismo en lo que se refiere a los ámbitos de competencia del gobierno vasco así mismo se compromete a presentar defender y desarrollar en los órganos donde el gobierno tiene representación las iniciativas necesarias para el pleno cumplimiento de este acuerdo y por ello lehendakari le preguntamos cuál es la propuesta de convenio que trasladará el gobierno vasco para garantizar el cumplimiento de este acuerdo en la fecha citada

señorías señor pastor el lehendakari como usted ha indicado en su intervención parlamentaria

las partes que en el ámbito de nuestra de competencia corresponden a los acuerdos suscritos

en el ámbito al que nos afecta esos acuerdos tienen una parte que hace referencia a principios de la reforma fiscal

de normas forales en juntas generales de cada uno de los territorios históricos hay otra serie de

y otra parte relativa también a la lucha contra el fraude fiscal

le tengo que manifestar las siguientes cuestiones esos acuerdos tuvieron luego una materialización

en un pleno del parlamento vasco del veintiséis de septiembre del año dos mil trece

en cuya sesión en el acuerdo número seis epígrafe primero a la que usted

se determina que por el parlamento que el gobierno y las diputaciones conformaran una comisión de lucha contra el fraude fiscal bien sobre ese aspecto

el mes de octubre el órgano de coordinación tributaria tomó el acuerdo de cumplimentar esa resolución parlamentaria explicitada en su epígrafe primero y por lo tanto esa comisión se creó

de noviembre las tres diputaciones forales y el gobierno vasco han ido nombrando

de lucha contra el fraude fiscal que como usted bien sabe tiene que estar conformada por personal técnico de cada una de las cuatro instituciones los técnicos especialistas en la materia han sido designados por los órganos competentes de las diputaciones forales y por el gobierno vasco

era la elaboración de un plan de lucha contra el fraude fiscal y los miembros de la comisión de lucha contra el fraude están en este momento en la labor de realizar los cometidos que le asignó esa resolución institucional de la cámara el pasado

indicarle también señor pastor que el segundo epígrafe de la iniciativa parlamentaria aprobada el veintiséis de septiembre hace referencia como usted al tema relativo al intercambio de información entre administraciones tributarias

una vez que el acuerdo entre los dos partidos se institucionalizó y esta cámara aprobó esa resolución parlamentaria

acordaran entre ellas la realización mediante convenios de cooperación interinstitucional la puesta en marcha

de información de datos tributarios así como la interconexión de datos tributarios son dos elementos importantes con dos parámetros

entre la administración institucional de la comunidad autónoma

con la agencia tributaria del estado y también los relativos a los acuerdos que existen desde mayo del dos mil once entre la agencia tributaria y la diputación foral de gipuzkoa donde se desarrolla intercambio de información y la interconexión

me consta y le puedo decir que las diputaciones están trabajando para entre ellas como dice la resolución parlamentaria acordar y formalizar los convenios de colaboración institucional

e impulsará y desde su posición institucional cooperará para que llegue a buen fin los acuerdos a los que usted ha hecho referencia que se institucionalizaron en las resoluciones parlamentarias
del pasado mes de septiembre gracias eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna

bien señor gatzagaetxebarria lo que sí le quiero decir es que los socialistas vamos a seguir insistiendo en este asunto porque nos parece importante no vamos a dejarlo
porque a su gobierno y especialmente al pnv hay veces que les gusta hacer referencia continua

y se refieren en cifras de millónes de euros que nosotros todavía no tenemos muy claro qué son si dinero aflorado si dinero recaudado ni tampoco las haciendas nos han dado explicaciones de cómo en qué plazos se ejecutan las reclamaciones correspondientes

la responsable de hacienda de gipuzkoa accedió a dar explicaciones aunque es verdad que con pocas concreciones el de álava ofreció excusas de agenda

ni siquiera se dignó a contestar a esta cámara donde decidimos cómo se gasta el dinero

y los inspectores de hacienda y todos los estudios académicos que se han realizado siguen manteniendo los mismo índices de fraude que venían dándose hasta la fecha

que créame usted que no vamos a cejar hasta que consigamos que la caja común de los vascos consiga recuperar una buena parte de ese dinero y no venimos aquí

decisión y ambición por parte de ustedes

esta batalla y que lo hagan con efectividad van a poder disponer de presupuestos

después de haber rectificado lo que preveían en el presupuesto inicial y por eso este presupuesto cuenta con novecientos millónes de euros más le pedimos le exigimos

de fraude fiscal eskerrik asko pastor jauna erantzuteko

simplemente el gobierno se ha comprometido a través del lehendakari a realizar las funciones necesarias para

y el gobierno dará cumplida información como se institucionalizó eskerrik asko

nosotros creemos que el tejido industrial vasco tiene un valor añadido

de muchos años de historia que han ido reforzando la imagen de los vascos en el mundo de una larga trayectoria de constancia y empeño por hacer las cosas bien

es que los vascos hoy somos gente fiable en el mundo gente apreciada y considerada

pero en un momento tan difícil como el actual hace falta más también que haya un empuje e iniciativa institucional para salir adelante hace falta

de la mejor manera posible y en el menor tiempo posible un escenario de tanta incertidumbre económica y en este momento hemos conocido hace pocas semanas

a empresas en condiciones ventajosas no vamos a discutir en este momento la legalidad o no de esa iniciativa para eso están los organismos competentes a nosotros nos toca discutir

su gobierno está haciendo todo lo que está en su mano para que las empresas vascas compitan en las mejores condiciones y por eso le preguntamos lehendakari cree que su gobierno está respondiendo a la competitividad exterior generando las mejores condiciones para retener

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señora quiroga hemos hablado muchas veces ya en esta cámara

desarrollada desde el departamento de desarrollo económico y competitividad y otros departamentos también del gobierno vasco en vinculación con lo que pueda ser el empleo o lo que es la actividad económica en todo caso

economía vasca para traer nuevas inversiones y yo quiero centrarme

mire le propongo seis indicadores objetivos para valorar realmente nuestra competitividad

nos encontramos en el veintiséis por ciento y estamos por encima de la media española

por encima también de españa en capacidad exportadora estamos en este año dos mil trece en una situación en la que vamos a superar como he dicho antes en la primera intervención

será por lo tanto el mejor año de nuestra historia en inversión

estamos por encima de la media española señora quiroga en inversión en formación universitaria

de la media española en graduados en ciencia y tecnología estamos por encima de la media en ocupación en sectores de alta o media tecnología nos situamos en el primer puesto de todo el estado señora quiroga así se mide la

de la economía señora quiroga de forma objetiva y mire para que no haya dudas con respecto a lo que estoy diciendo recomiendo que miremos entre otros muchos estudios también el estudio del mapa de ventajas competitividad por comunidades autónomas para el próximo año dos mil catorce que ha publicado el bbva le recomiendo

y que mire cómo analiza doce indicadores objetivos para las diecisiete comunidades autónomas del estado español y ofrece dos rankings diferenciados

y con la visión a corto plazo el primer lugar del ranking lo ocupa euskadi y otro ofrece la visión global de ventaja comparativa

en el ranking euskadi la economía vasca señora quiroga es competitiva

gracias señora presidenta lehendakari yo me voy a leer ese informe

también se empieza a leer los informes que hacen los agentes que están trabajando en euskadi que representan a los empresarios a los que generan

a esta situación yo le ofrezco eso escúchelos

cuáles son sus dificultades y entonces empezaremos a entendernos porque todos esos datos que usted ha dado usted sabe que en el ranking en competitividad hemos bajado y lo sabe

por eso lo que yo aquí quería preguntarle lehendakari es si su gobierno está poniendo al servicio de quienes generan empleo en euskadi toda la capacidad

eso es lo que aquí estamos hablando porque por encima de otras responsabilidades que le corresponden a usted esta debería ser la prioridad la de

la de ser útil y la de ser capaz de poner soluciones encima de la mesa y vaya por delante que no creo que la mejor manera de salir de la crisis en este país sea la que cada uno haga la guerra por su parte no creo que ese sea el camino sinceramente porque desde el partido popular creemos

la manera de salir de esta crisis es desde la colaboración que nos refuerce a todos un modelo de crecimiento y salida de la crisis en que lo importante sea cómo sumamos y no cómo restamos nuestras empresas

hoy a un mercado globalizado de enormes dimensiones donde las oportunidades de negocio están a miles de kilómetros de distancia necesitamos ser cada día

más fuertes y solo se consigue eso desde la suma

trabajemos juntos y de verdad por fortalecer la posición de las empresas vascas y comparta conmigo que el futuro de nuestra economía pasa

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora quiroga insisto en que euskadi es más competitiva que la media española pero no me conformo

y usted hace referencia a estudios y usted hace referencia a la relación con empresas le aconsejo que sea usted quien tenga relación con las empresas y con las organizaciones empresariales más allá de dedicarse a leer los titulares de determinados medios de comunicación y por ejemplo tome usted la referencia de lo que ayer mismo se publicaba

un cuatro coma seis por ciento de empresas en la comunidad autónoma del país vasco si eso no es suficiente garantía de competitividad

dígame otra cosa en todo caso nosotros vamos a seguir trabajando y pactando acuerdos usted plantea colaboración

acuerdos también vamos a seguir trabajando con su partido acuerdos para dar estabilidad a los presupuestos para aprobar una reforma fiscal para aprobar un plan de reactivación

inversiones concertadas con las tres diputaciones para garantizar la financiación de circulante a las pymes y personas autónomas para poner en marcha el fondo euskadi

a la industria inversión innovación internacionalización eso es colaboración que está ofreciendo el

euskadi está saliendo de la recesión señora quiroga lo estamos consiguiendo ahora antes había menos exportaciones ahora hay más antes la economía decrecía ahora crece

buenos días a todas y a todos señores consejeros señor lehendakari le pregunto por el contenido de las reuniones secretas que usted ha mantenido

los últimos meses le pregunto porque apenas sabemos nada y queremos saber en aras a la transparencia se lo preguntamos por escrito y ciertamente apenas nos respondió nada no queremos que nos informe únicamente de los acuerdos

sino también de las propuestas concretas que usted haya podido realizar

el secretismo y la opacidad no son cosas que nos gusten señor lehendakari preferimos la transparencia alguna cosa hemos leído en prensa pero queremos que nos lo explique usted en sede parlamentaria

y se lo explique a los ciudadanos su secretismo y el secretismo del presidente del gobierno de españa son ciertamente muy sospechosos

en la que se están produciendo excarcelaciones injustas y apresuradas de presos de eta señor lehendakari

un plan para la excarcelación masiva de presos de eta señor lehendakari

específico para modificar la política penitenciaria y beneficiar a los etarras le hizo algún tipo de propuesta concreta se la entregó

puede informar acerca de ella le preguntamos si efectivamente presentó algún tipo de plan para la excarcelación masiva de presos de eta y si puede entregarnos ese plan si existe ese plan y también

sí incluso discreto ya me gustaría a mí que todo lo que es el abogar por cuestiones discretas como hago se mantuvieran en discreción muchas veces y no por mí desde luego aquello que apelo a la discreción

le reconozco que con el presidente del gobierno español me he reunido en tres ocasiones como lehendakari del gobierno vasco en enero

señor maneiro obedecen a una relación institucional y hemos abordado

que afectan a la relación entre los dos gobiernos hemos abordado también la realidad social la realidad económica la realidad política

señor maneiro de paz y de normalización en la convivencia en euskadi

como lehendakari he hecho entrega al presidente del gobierno español de diversos documentos

lo que afecta a la relación entre gobiernos gobierno vasco y gobierno español que no es solamente el aspecto al que usted se quiere referir

y espero entregarle también el definitivo este documento además el del plan de paz y convivencia incluye una iniciativa la número ocho en relación a la política penitenciaria

he planteado siempre una visión global que incluya el reconocimiento y la reparación de víctimas la memoria el reconocimiento del daño causado

posterior a la firma del documento cuando se me preguntó nunca he planteado un documento con un plan de excarcelaciones mire lo que yo he planteado

fuera de lo que hayan sido las reuniones han sido reflexiones y aportaciones basadas en el análisis de la situación y de las posibilidades también en el caso de la política penitenciaria se propugna la aplicación estricta de la legislación penitenciaria ordinaria propuesta no es nueva señor maneiro es la que he defendido siempre

como sonriendo no sé exactamente por qué me parece que es un tema lo suficientemente serio y sí sí hay secretismo

usted ha hablado de que determinados asuntos salen de manera tergiversada en los medios de comunicación es decir que los medios de comunicación tergiversan si usted fuera todo lo claro que dice que quiere ser

los ciudadanos sabrían perfectamente qué es lo que usted habló

no lo sabemos porque hay secretismo porque usted no cuenta todo porque no sabemos la verdad

que se tergiversen si usted fuera todo lo claro que debería ser no habría ninguna opción a ningún tipo de tergiversación sabríamos los hechos de manera clara

bueno lo hemos escuchado en los últimos tiempos la persona que se sienta a su derecha recientemente hablaba de política penitenciaria vengativa o incluso criminal a nosotros nos da la sensación

quizá sea también una tergiversación usted habló de política penitenciaria vengativa ustedes hablan cada vez más como los batasunos como los batasunos cada vez hablan más ustedes

entregó algún tipo de plan concreto para la excarcelación nosotros tenemos ciertamente sospechas a ustedes les preocupa más los presos

y nosotros en todo caso vamos a seguir defendiendo que no haya ningún tipo de impunidad esto no es venganza esto es defender la justicia sea todo lo claro

eskerrik asko legebiltzarburu andrea mire señor maneiro el mejor indicador de que usted quiere seguir empeñado en este tema por encima de todas las explicaciones que uno le quiera dar es

insisto en que he hecho entrega al presidente del gobierno español de diversos documentos y también de diversos documentos relacionados con la paz y la convivencia insisto en que lo considero una obligación y se aborda

el tema del desarme y el desmantelamiento de eta se aborda también el tema de las víctimas y la necesidad de memoria verdad y justicia de la reparación y el pago de indemnizaciones

y se habla como he dicho de algo que también consideramos necesario la flexibilización de acuerdo al ordenamiento jurídico de la aplicación de la política penitenciaria he sido miembro de este parlamento señor maneiro antes de esta legislatura he presidido la comisión de derechos humanos que ya realizaba

la única diferencia es que ahora estamos ante un nuevo tiempo aunque usted se niegue a admitirlo señor maneiro y una puntualización para acabar

porque la convivencia en euskadi es el futuro de euskadi he hablado con el gobierno español he planteado una propuesta global para la paz y la convivencia lo he hecho y lo voy a hacer

señora presidenta señor lehendakari le hemos hecho una pregunta porque usted hace unas semanas en un foro público aseveró que en el año dos mil catorce se iba crear empleo en un principio

porque no encontrábamos el sustento el apoyo documental afirmación es más todo lo que hasta ahora tenemos registrado en esta cámara o en las iniciativas políticas competencia de este gobierno para

o para otro tipo de actividades en materia económica y de empleo establecen algunas directrices y algunos planteamientos distintos diferentes a los que usted planteaba en ese foro en realidad una vez que nos llamó la sorpresa

la noticia si es positiva nosotros no queremos enturbiarla con ningún argumento o con ningún elemento negativo por eso lo primero que queremos hacer es darle a usted la oportunidad en esta tribuna de que esa aseveración de que dos mil catorce se va a crear empleo la pueda ampliar la pueda documentar nos pueda ilustrar sobre ella y será entonces cuando nos conformaremos una opinión y le daremos también en esta tribuna nuestra opinión al respecto

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor prieto hago referencia también como usted hacía en su formulación de la pregunta a lo que afirmé en la jornada de apd el pasado veinte de noviembre y que también hoy en la intervención primera de esta mañana

y lo que dije en aquel momento es lo siguiente estamos culminando la travesía del desierto y podemos mirar al futuro con mayor confianza

suscrito con el partido socialista de euskadi la innovación la inversión y la internacionalización son recursos al servicio de una reactivación económica que pueda generar crecimiento sostenido desde comienzos de dos mil catorce y empleo estable a finales de año esto es lo que literalmente dije

me pide usted el criterio del gobierno en todo caso y hoy tres semanas después

porque ese plan de reactivación económica que citaba insisto está acordado

muy importante segundo porque euskadi va a contar con una gran estabilidad institucional y presupuestaria el próximo año dos mil catorce gracias al pacto alcanzado también con su propio partido en esta institución y en otras instituciones al que se ha sumado también en el caso del gobierno vasco el partido popular y gracias también como digo

que la diputación de gipuzkoa tenga también con presupuestos aprobados y tercero porque

para el gobierno vasco que su partido insisto ha acordado incluye precisamente la previsión que adelanté hace tres semanas y yo hace tres semanas estaba trabajando también con lo que era ya el proyecto de presupuestos y es que el próximo año tendremos crecimientos sostenido y la tasa de paro será inferior a la del presente año

va a generar confianza estoy seguro y crecimiento en dos mil catorce lo reitero mejora el entorno económico y creo que podemos mirar al nuevo año con confianza señor

esa aseveración que diera datos mire yo le voy a decir

después incluso de que usted hiciera esta afirmación y que se han hecho además en sede parlamentaria decía el señor gatzagaetxebarria el cinco del once es decir hace unos días soy muy responsable y soy muy prudente este año destruimos empleo se referirá al dos mil trece y también al siguiente

y añadió si dijera lo contrario estaría operando de manera no responsable en el pleno de totalidad el señor gatzagaetxebarria volvió a decir

y que con esos estándares de incremento no iba a ser suficiente para generar empleo neto en el año dos mil catorce en las directrices económicas tanto para el dos mil trece que ya se planteaban

para hacer este proyecto de presupuestos se llega a en datos decir que en el año dos mil catorce

incluso en el año dos mil trece se ha jugado con una orquilla

y eso que normalmente cuando se hacen previsiones en directrices económicas para hacer proyectos presupuestarios pues se suele acudir a que al final al final al final siempre todo estará mejor

casi todas las previsiones han ido siempre a peor claro la pregunta es si el señor gatzagaetxebarria dice que se van a destruir

y usted dice que se va a crear empleo en el año dos mil catorce no concuerdan estas

del gobierno y a mí no me parece esto serio a mí no me parece que la publicidad y la propaganda en un tema tan sensible y dramático como es el empleo para la ciudadanía pueda ser objeto

desde una responsabilidad institucional tan importante como es el lehendakari o como es el propio gobierno que se hagan simplemente para tranquilizar o contentar de manera artificial a la ciudadanía precisamente porque el partido socialista ha sido responsable y comprometido con la situación de este país ha formulado acuerdos y ha hecho acuerdos con ustedes acuerdos de fondo y acuerdos presupuestarios acuerdos para tratar que haya creación de empleo y que se salga de esta situación

creación de empleo no significa que lo uno y lo otro son contradictorios

yo soy muy realista y soy muy conocedor de las dificultades del momento y en esa misma jornada que he citado aquí

iban a ser dos ejercicios duros y difíciles y usted me pregunta por las previsiones de empleo

no es para echar las campanas al vuelo desde luego pero vamos a mejor señor prieto

en noviembre es de ciento setenta y cuatro mil setecientos personas hay quinientos ochenta y uno personas menos registradas

además usted ha dado el visto bueno y espero que así lo sea también el próximo día veinte a unos presupuestos que estima un crecimiento del cero coma nueve por ciento y una cifra de desempleo del catorce coma dos por ciento para el año dos mil catorce cuando cerraremos este año en el catorce coma cuatro por ciento vamos a mejorar sin ninguna duda señor prieto ni estoy satisfecho

solo digo que las medidas que hemos adoptado van a dar sus frutos que hemos acometido la consolidación fiscal

que hemos puesto los cimientos y en este momento estamos saliendo de la recesión hemos acordado una serie de medidas de reactivación económica y que la dirección de la economía vasca es la adecuada ahora se trata de imprimirle más velocidad yo mantengo la confianza señor

presidenta señor lehendakari hago un pequeño resumen de las cosas que han venido ocurriendo en las últimas semanas

excarcelaciones de presos de eta derogación de la aplicación

inicio de excarcelaciones de presos etarras realización del primer homenaje público

para pedir que este parlamento muestre su cercanía con las víctimas del terrorismo

considerar que efectivamente vulneran la ley de víctimas vasca y la ley de víctimas nacional la mesa del parlamento vasco impide

arbitraria de la mesa del parlamento vasco esta iniciativa todavía no se ha podido debatir se debatirá la próxima semana siguen produciéndose

una pregunta oral en un pleno de control le pregunto qué va a hacer usted y que va a hacer el gobierno vasco para impedir estos homenajes usted niega

cuando ya se había producido al menos uno es decir usted miente y se lava las manos no solo eso ataca a quien le llama la atención sobre un hecho gravísimo

y efectivamente vuelve a ocurrir posteriormente se siguen produciendo homenajes públicos a presos de eta excarcelados

homenajes que recientemente el gobierno vasco ha calificado de acogidas calurosas la pregunta que le hago es si usted considera

correctamente su trabajo ante los homenajes a etarras excarcelados si usted ha estado a la altura si usted como lehendakari

respondido como respondió hace apenas tres semanas

absolutamente grave como es la realización de homenajes a presos de eta si usted a la altura y si su gobierno ha estado a la altura nosotros evidentemente pensamos que no han estado a la altura en absoluto

está usted empeñado en mantener viva una polémica al menos estéril

de derechos humanos del veintiuno de octubre del dos mil trece se han producido la excarcelación de sesenta y uno presos

sujetos a la aplicación de esa sentencia europea para usted por lo visto

pero para la justicia insisto para la justicia son ciudadanos libres es evidente que no participamos del mismo celo político a la hora de valorar las decisiones de la justicia que a usted le gustaría impartir y aplicar de otra manera la ertzaintza señor maneiro

vela en todo momento por la legalidad y activa los dispositivos legales a su alcance

los homenajes como usted dice están perfectamente tipificados en el código penal y esos son los homenajes no lo que usted califica como homenajes por tanto

ha elaborado los informes y en su caso los ha remitido a la audiencia nacional cuando así lo ha considerado eskerrik asko eskerrik asko beltrán de heredia

gracias presidenta señor lehendakari se ha vuelto

la pregunta era dirigida al lehendakari y usted se ha vuelto a lavar las manos y no ha querido responder

cuando ya se había producido al menos uno señora consejera la pregunta no es sobre la doctrina parot de qué usted ha venido a hablar

hemos hablado de homenajes públicos que ha habido en euskadi y que suponen la vulneración de la ley

y un insulto a las víctimas del terrorismo de esto estamos hablando no de la doctrina parot en absoluto

estamos hablando de los homenajes que ya ha habido y le hemos venido preguntando al gobierno qué iba a hacer para impedirlos y qué ha hecho el gobierno para impedirlos nada negar los hechos lavarse las manos y mentir esto es lo que ha hecho el gobierno vasco ante los homenajes públicos no son acogidas de familiares ni acogidas privadas son homenajes públicos suponen un insulto a las víctimas del terrorismo

esto es lo que ha ocurrido por lo tanto les ruego a todos ustedes que no vengan aquí a mentir nuevamente ha habido homenajes y ustedes no han hecho nada

y especialmente el lehendakari hoy se ha vuelto a lavar las manos a ni siquiera querer responder

eskerrik asko insisto señor maneiro la justicia es la justicia y el código penal tipifica perfectamente qué son homenajes qué son recibimientos y qué no lo es

no estamos además para darle el gusto a usted estamos para cumplir con la ley y estamos para garantizar la seguridad a euskadi para eso está la ertzaintza no para darle el gusto a usted la justicia tanto europea como la española ha considerado que

recibimientos en las calles a la puerta de las prisiones en las aceras recibimiento de familiares de amigos efectivamente la ertzaintza sabe perfectamente distinguir entre un homenaje

no le quepa ninguna duda acusar de mentir quien está mintiendo es usted en todo caso usted pretende que apliquemos

no de lo que dice la ley por tanto insisto además esta cuestión que tanto debate y tanta polémica está despertando en ciertas filas políticas

han informado nada más que en tres casos de la salida de presos de eta por tanto no debía preocuparles demasiado que

ese riesgo yo de todas maneras no voy a seguir alimentando este tipo de debates estériles no voy a seguir alimentando

no aplicaría la ley no intentaría que el tipo de condena fuera otra en fin

la ley es la ley y nosotros respetamos la ley la ley con mayúsculas no la ley que

gracias presidenta doy por hecho que a esta pregunta tampoco va a responder

será respondida esta pregunta por la consejera de seguridad yo en todo caso espero que el gobierno vasco deje de mentir

alimentar algún tipo de polémica o algún tipo de debate no sé si quieren hacer esto o no quieren hacerlo yo lo que les pido es que no falten a la verdad que no digan cosas que no son nosotros queremos que se cumpla la ley la legalidad vigente y lo que ustedes han hecho ha sido negar hechos perfectamente demostrados ha habido homenajes públicos a presos de eta

actos de kale borroka o tampoco ha habido actos de kale borroka señora consejera señor lehendakari no

qué es lo que ha hecho el gobierno para impedirlos qué es lo que ha hecho la ertzaintza para impedirlos para impedirlos sí para impedirlos

y para después buscar a los responsables de esto es de lo que estamos hablando

ustedes no pueden negar estos hechos se han producido en distintos puntos de la geografía varios ataques de kale borroka quemas de contenedores

ataques a distintas sedes de distintos partidos políticos por

octavillas en esa misma línea preguntamos sobre esto porque es una cuestión importante para garantizar la convivencia no para incordiar al gobierno no para incordiar al lehendakari

criticar los ataques habidos a diferentes sedes de diferentes partidos políticos todos ellos democráticos y diferentes actos de kale borroka

y qué va a hacer en el futuro para impedirlos son una violencia inaceptable un ataque absolutamente inaceptable a los más básicos principios

pediría al lehendakari pediría a la consejera que no quite importancia a este tipo de cuestiones y que tampoco venga a decirme aquí que utilizo este tema para no sé qué ruego por lo tanto que no quite importancia a estos actos que nos parecen ciertamente graves obras por cierto obra y ataques realizados por

algún consejero acertó en la definición los fachas de amaiur bildu

han impulsado estos ataques de kale borroka queremos saber qué medidas va a adoptar el gobierno

al rebrote de la violencia callejera eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko beltrán de heredia andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea efectivamente no vamos a quitar importancia a ningún acto de violencia sea del tipo que sea ninguna pero ninguna importancia es muy importante

se han quemado dos banderas españolas una europea ha habido algunas barricadas cortes de carretera ataques a entidades bancarias se ha producido dos cortes de catenaria se han quemado algunos contenedores

sedes de partidos políticos del partido popular y también del pnv y el último día el día veintinueve de noviembre en la sede del partido popular de barakaldo recibió un impacto

algunos de estos actos han estado asociados a través de pancartas pintadas y panfletos efectivamente a las protestas de la situación de los presos en la cárcel de sevilla segundo otros actos violentos no han dejado

en todos los casos identificados como violencia callejera o kale borroka ha abierto diligencias ha elaborado los correspondientes atestados

ante estas expresiones de violencia desde el compromiso del gobierno con la sociedad promoveremos siempre y exigiremos una condena de este tipo de actuaciones

y trabajaremos para fortalecer los valores democráticos compromisos que no tenga ninguna duda asume el departamento de seguridad y asume la

una eficacia demostrada en la persecución de estos delitos de violencia en la detención de sus responsables para ponerlos a disposición de la justicia

adopta la ertzaintza que adopta el departamento y este es el camino que vamos a seguir

sí gracias consejera efectivamente esto es lo que queremos compromiso del gobierno y de la ertzaintza para impedir

que hayan realizado estos actos y no quitar ningún tipo de importancia a este tipo de actuaciones en todo caso yo creo que no se trata tanto de rogar

los actos de kale borroka o mucho menos que sean ellos mismos quienes detengan a sus autores amigos como algún lumbrera ha propuesta recientemente sino sobre todo al gobierno vasco contundencia y es lo que nosotros le pedimos usted recientemente calificaba las últimas acciones de esporádicas

para definir estas acciones como esporádicas y no organizadas porque a nosotros nos parece que sí que están perfectamente organizadas

algún dato que nosotros no tengamos en todo caso poner en marcha la ertzaintza para impedir estos actos gracias

una larga experiencia y por desgracia muy ejercitada para resolver este tipo de situaciones y para diferenciar lo que es violencia callejera de lo que es o se ha conocido con el nombre de kale borroka por tanto en ese aspecto esté

sabe realizar su trabajo y realiza su trabajo adecuadamente el compromiso del gobierno con la sociedad vasca no es otro que el de promover insisto

institucional y social una condena social firme de estos actos de violencia abogar

y la convivencia y trabajar en la defensa de los valores democráticos estos compromisos como le he dicho antes asume el departamento

y asume la ertzaintza desde su labor policial desde

en la persecución de este tipo de delitos y de otros la ertzaintza

experiencia y conocimiento está permanentemente alerta ante cualquier vulneración

violencia que siempre será inaceptable condenable y que la

y condenados por el daño causado como le decía este es el camino

en la que van la ertzaintza y el propio gobierno eskerrik asko eskerrik asko

señor erkoreka el terrorista francisco javier martínez izagirre alias javi de usansolo condenado por el atentado que costó la vida al niño de tres años fabio moreno asla

con el lanzamiento de cohetes y vítores a favor de la banda terrorista eta además este pájaro asesinó también

guardias civiles por lo que ha cumplido veintiuno años de cárcel lo que viene a ser unos cinco años por asesinato este es el precio por asesinar cinco año por asesinato un centenar de personas

javi de usansolo al que dieron la bienvenida con el lanzamiento de cohetes e hicieron un pasillo de honor portando antorchas ikurriñas banderas a favor del acercamiento de los presos de eta etcétera y al bajar del vehículo

de otra manera para darle las gracias por la acogida javi de usansolo fue abrazado

y jaleado por sus allegados pero sobre esto

cómo les reciben o las motivaciones que tienen quienes reciben no solo le quiero interpelar señor consejero yo no le tengo a usted por alguien frívolo

más bien todo lo contrario por eso sorprende especialmente que usted calificara este hecho

jurídicamente penable como un caluroso acto de acogida en serio cree usted esto señor erkoreka cree que alguien que ha asesinado a un niño de tres años

con antorchas con vítores en el seno de nuestra sociedad que su gobierno dirige y preside

andrea señor sémper permítame dedicar la primera parte de intervención a hacerle dos consideraciones le agradezco que haya

mire este consejero que le habla nunca ha considerado que en la política

y mucho menos además en cuestiones importantes como la que usted plantea aquí se podrá compartir o no lo que este consejero dice o hace pero de frivolidades por regla general nada por tanto le agradezco que haya matizado

yo comprendo la incomodidad en la que se encuentra usted y su grupo parlamentario

los vientos que han propagado durante tanto tiempo se les vuelven en contra en forma de tempestades cuando se van ustedes a madrid a una manifestación y la multitud les abuchea los mismos que están lanzado vítores a mayor oreja al son de presidente presidente presidente

las incomodidades en política sobre todo cuando son consecuencia de los vientos que uno mismo ha provocado son

en este caso con el gobierno y con este consejero por tanto

siga la recomendación en serio y gestionen esa incomodidad como mejor puedan porque son tempestades que proceden de los vientos que ustedes mismos han propagado no me haga a mí imputaciones

en serio que ni en este ni en otros temas frivolizo pero en este de manera especial

lamento que confirme que para usted son actos de calurosa acogida mire señor erkoreka le puedo asegurar que si alguien tiene claro que con este tema no se puede frivolizar somos nosotros ayer se cumplían trece años del asesinato a un compañero nuestro por ejemplo sabe lo que pasa es que nuestro calendario está lleno de efemérides por lo tanto no

ni a excompañeros yo le estoy hablando como un representante de los ciudadanos vascos

es algo digno para la sociedad vasca y es un reflejo de la sociedad vasca real y es algo que este gobierno debe responder con contundencia con determinación o calificándolo como acto de calurosa acogida es lo único sobre lo que le estoy interpelando

las palabras se convierten en armas arrojadizas que no solo propician el encuentro sino que blindan el antagonismo pues bien

erkoreka demuestra muy poco por eso yo quiero saber si rectifica

ya ha dicho usted que no es fruto de una frivolidad o si su gobierno de una vez por todas va a entender que tenemos que construir el futuro de euskadi sobre unos cimientos sólidos que no les den a estos señores

si vamos a construir unos cimientos sólidos compartidos entre los cuales

no tienen pase eso es lo que tenemos que construir entre ustedes y nosotros pero con ese tipo de manifestaciones se lanza un mensaje equivocado a la sociedad vasca

señor sémper no se da cuenta usted de que con tanta teatralización con tanta sobreactuación están acabando haciendo el ridículo no se da cuenta

ninguna insinuación ninguna bromita de ese sentido que no le voy a tolerar

mire de tanta sobreactuación ustedes están incurriendo en el ridículo fíjese lo que ha hecho su compañero el delegado del gobierno

y cuando presentó sus cuatro informes de a cada tres líneas a la audiencia nacional

la audiencia nacional los echó para atrás porque no tienen ningún sustento para nada

que no servían para que la fiscalía pudiera dar el más mínimo paso de qué me está hablando

entre lo que es la acogida incluso si quiere calurosa a un amigo o a un familiar que cometió un delito que fue condenado que cumplió condena durante veinte veinticinco o veintiocho años

y lo que es la exaltación del delito que ese amigo o familiar ha podido cometer le voy a poner un ejemplo que va a entender perfectamente imagínese usted

que coge el teléfono para llamarle a un delincuente y le llama

está con eso enalteciendo y exaltando el delito que ha cometido la persona con la que habla quiero suponer que usted piensa que no verdad porque si no eso si que sería una auténtica noticia esa es la diferencia entre acoger a un familiar o un amigo y una exaltación del delito que ha podido cometer esa persona

salvo que usted me diga que efectivamente quien llama amiguito del alma a un delincuente
está exaltando o enalteciendo el delito que ha podido cometer esa persona barrio jauna isildu mesedez le puedo poner más ejemplos si

que con sms hacen gestos de amistad con delincuentes espero que no prefiera que no

sí gracias señora presidenta señor lehendakari consejeros señorías

agrarias y marítimo pesqueras en nuestra comunidad autónoma la gestión de la formación profesional agraria desde el traspaso de esta competencia

la náutico pesquera vendría más tarde hablamos de los centros de arkaute derio fraisoro en el inicio de los ochenta

en numerosas ocasiones desde el grupo popular habíamos manifestado la necesidad de que la formación profesional

formando parte de la red de centros de formación profesional

de este gobierno aprovechando las sinergias que la pertenencia

de centros de formación le puede aportar además de las relaciones y alianzas que se pueden establecer con otros sectores productivos próximos todo ello con el objetivo principal de ofrecer una formación profesional agraria

donde la innovación va a ser el eje sobre el que pivote la actividad agroforestal y de la pesca nunca ningún grupo de esta cámara manifestó el más mínimo interés porque esto fuera así ni siquiera valorar si pudiera tener algún aspecto positivo

los gobiernos nacionalistas y el partido nacionalista vasco

según sus criterios y esto durante más de treinta años todo ello claro está por el bien del sector primario como no podía ser de otra manera en noviembre de dos mil once durante el gobierno socialista las consejeras de medio ambiente planificación territorial agricultura y pesca y de educación universidades e investigación anuncian la intención de impulsar la transformación de las escuelas agrarias y náutico pesqueras adscritas a una empresa pública y mercantil como era

en centros de integración de formación profesional y adscritos al departamento de educación universidades e investigación alegando que esta decisión responde a la solicitud

de trabajadores se inicia el proceso de traspaso proceso

los trabajadores de los centros seguramente porque este proceso no se hizo de la mejor manera posible también porque todo cambio levanta dudas y también por qué no decirlo porque el partido nacionalista vasco no veía esto con buenos ojos

aceptaban que podía ser bueno y discrepaban del método con el decreto

una vez asumido el servicio de formación agraria y náutico pesquera por el departamento de educación se integra el personal docente de los centros y el no docente también además de otras normativas que

integración se mantiene el vínculo entre el departamento con competencias en agricultura y pesca con lo centros manteniendo el área de actuación para la promoción

la que se viene llamando formación para el empleo como decía probablemente este

que cuando llega el nuevo gobierno la integración es prácticamente una realidad así se encuentra usted señora consejera y su equipo el departamento

no le tembló el pulso para incluir entre sus funciones la dirección y coordinación de la formación agraria y náutico pesquera pero este decreto decía algo más dice en su disposición adicional cuarta con anterioridad al treinta y uno de agosto de dos mil trece mediante orden conjunta

desarrollo económico se efectuará el traspaso de los medios adscritos a la gestión de los centros docentes de derio arkaute fraisoro pasajes y bermeo orden por cierto que yo sepa no ha visto

este decreto se hace sin testar el sentir de los trabajadores

quedando en el olvido los recelos iniciales lo que vuelve a provocar con el decreto que usted publica un nuevo

y náutico pesqueras y de una u otra manera nos transmitieron

su preocupación ante este decreto su oferta señora consejera no es bien recibida entre otras cosas porque supondría dejar

les ha generado bastante inseguridad y sobre todo en estos momentos de crisis

a supuestamente una fundación pues da bastante frío si la actuación del anterior gobierno en este traspaso de funciones

porque yo lo valgo tampoco es para premio más bien parece un órdago sin cartas señora consejera desde el grupo popular entendemos que la formación agraria y náutico pesquera debe estar orientada a preparar profesionales para un sector inmerso en una fuerte tendencia en innovación

entendemos señora consejera que también este gobierno tendrá en esa nueva estrategia para la formación profesional agraria o la formación profesional en general contemplará que

señora consejera lo que queremos saber es saber cuál es el propósito del gobierno para el futuro de la formación agraria y náutico pesquera en la comunidad autónoma vasca creo que

debe dar una respuesta y generar estabilidad en los centros de formación profesional eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko

eskerrik asko presidente andrea señora lópez de ocariz como usted bien sabe y comentaba el órgano competente en materia de formación agraria y náutico pesquera ha venido siendo desde la creación del gobierno vasco en el año mil novecientos ochenta y uno hasta el dos mil doce el departamento de agricultura y pesca ostentaba esa competencia que no siempre se ha llamado así esta situación cambió durante un breve periodo tras la publicación del decreto cinco barra dos mil doce de veinticuatro de febrero

de tal forma que del departamento de agricultura desapareció la formación agraria y náutico pesquera siendo sustituida por la promoción de la capacitación profesional agraria y marítimo pesquera y fue el departamento de educación quien asumió esta competencia

era en principio la desaparición de las escuelas de formación agraria de arkaute

transformándose en centros integrados de formación profesional bajo la dependencia directa del departamento de educación en cualquier caso señora lópez de ocariz

o se han considerado como parte de su patrimonio me parece exagerar en exceso y desde luego

en el inicio de esta legislatura el uno de marzo volvemos a atribuir al departamento el departamento competente la materia

y me va a decir usted que dónde mejor no solo por la competencia agraria náutico pesquera donde está la innovación tecnológica donde están los centros asignados

donde se encuentran el emprendimiento donde está la internacionalización porque

de una petición sindical o estamos hablando de la mejor formación de nuestros alumnos y alumnas de qué estamos hablando nosotros desde luego es una escuela de formación y estamos hablando de lo mejor para nuestros alumnos y alumnas no hay por otra parte que dudar que la formación que la situación actual se rige

la ley diecisiete barra dos mil ocho de política agraria y alimentaria hasta la publicación de esa ley solamente existían disposiciones decretos pero en este momento la ley atribuye un nivel superior

se eleva a rango legal y por tanto en ese caso la competencia de estas escuelas

donde se encuentra la competencia agraria y pesquera por tanto es a través de este departamento donde se va a llevar esa formación insisto formación que esperamos sea la mejor para nuestros alumnos y alumnas siempre en colaboración

que garantiza la prestación del sistema educativo vasco no solos sino con el departamento de educación pero haya donde se encuentra la competencia manteniendo las escuelas que usted bien conoce agraria de derio la de arkaute el instituto pesquero de pasaia fraisoro y la escuela de formación náutico pesquera de bermeo en qué procedimiento nos encontramos

es cierto por una parte tenemos que hacer frente a cómo

puesto que la ley de patrimonio entiende que el cambio de adscripción de los bienes afectados como usted bien conoce toda vez que las funciones han sido ahora asignadas a nuestro departamento debe formalizarse expresamente también en el régimen presupuestario debe

para que los recursos que se encuentran en el departamento de educación sean asignados a nuestro caso y ahora entramos en el régimen de personal que es donde nos hemos encontrado la dificultad y no se lo niego

nuestra intención inicial atendiendo a las demandas del personal que también consideramos que son importantes al personal docente ha sido que el colectivo continuara en el departamento de educación como personal laboral docente y que el personal no docente continuará adscrito al departamento que presido en este momento

de esta intención sin embargo dada la dificultad que nos encontrábamos y trabajando también con el departamento de función pública hemos llegado a una conclusión diferente y es que esto no se podía llevar a cabo de esta forma y lo vamos a realizar de otra

considerando la premisa inicial reiterada de que las escuelas

y la formación de calidad se va a dar desde nuestro departamento las escuelas agrarias

y van a estar bajo el departamento de desarrollo económico y competitividad y van a ser consideradas dentro de la dirección de desarrollo rural y litoral y políticas europeas del gobierno vasco ahí es donde se va a ubicar todo el personal a partir de ahora estamos empezando a trabajar

más eficiente posible manteniendo informados a todos los ámbitos implicados evidentemente en los centros de formación y también a esta cámara buscando siempre la mejora

señora consejera según su teoría la formación profesional

innovación y el emprendimiento porque por su teoría también la formación debería depender de su departamento esto no tiene ningún criterio como dice usted de innovación y de estar más próximo a la innovación el emprendimiento y es por lo que le decía

en la mente por lo menos porque las han hecho pues eso codo con codo el partido nacionalista vasco y el gobierno y por lo tanto es una realidad

usted habla de los trabajadores y efectivamente pero es que hay muchos jóvenes que a la hora de elegir dónde ir a la formación profesional no entienden ni comprenden por qué no pueden estar dentro de educación no lo entienden eso se lo digo yo

y por qué no está dentro del sistema junto con el resto de formación profesional eso por lo tanto señora consejera desde nuestro punto de vista la formación profesional agraria debería seguir dentro de educación

alejada de la innovación o del emprendimiento como tampoco está alejada la formación profesional

por ejemplo por lo tanto una vez más lo que creo que

rifirrafe lo que está primando es más el criterio político que el criterio de una buena educación para estos profesionales del futuro

señora consejera además educación ya tiene experiencia en centros de formación agraria

departamento y no creo que tengan una peor formación que los de derio arkaute

ni de menor calidad por qué esta diferencia por qué señora consejera

tema yo es que creo que de verdad son unos

y que en nada están favoreciendo a la formación profesional al conjunto de trabajadores y también al conjunto de alumnos que están en esas escuelas creo de verdad

la mejor formación profesional también en la agraria y creo que desde educación se puede hacer creo que se puede hacer igual que tenemos una buena formación profesional

estando en educación por lo tanto señora consejera tan difícil es hacer un racionamiento quitando el perfil

que tanto empeño han tenido durante más de treinta años con estas escuelas agrarias tantísimo empeño de verdad nosotros creo que

usted hace referencia al cumplimiento del articulado de la ley de política agraria y alimentaria señora consejera usted tiene interés en el articulado de esta ley los días pares

hay artículos que esta cámara le ha pedido que los desarrolle y seguimos sin conocer el desarrollo

pero de verdad creo que flaco favor le estamos haciendo a la formación profesional

con mayor profundidad y sean

nacionalistas que tanto les han influido a la hora de configurar estas escuelas y céntrense más en una formación profesional adaptada al siglo veintiuno no al modelo de los años ochenta

ustedes tanto añoran por favor miren al futuro eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko señora lópez de ocariz me dice que es que insistiendo que las escuelas las hemos considerado patrimonio nuestro y dice y esto es así y como conclusión sustentada en qué datos

las conclusiones se obtienen sobre datos y sobre análisis rigurosos vamos a ser un poco serios por favor

usted me dice que yo me atengo a la ley los días pares impares según me toca y usted cuándo se atiene porque esta parte de la ley no le gusta

esta no le gusta nosotros estamos cumpliendo la ley y no estamos haciendo nada más y si pudiéramos contrastar el modelo que usted dice del siglo veintiuno estando la formación en educación frente al que se ha llevado acabo

pues quizá pudiéramos obtener alguna conclusión pero es que me está diciendo acaso que la formación que se ha llevado acabo hasta el dos mil doce no es moderna no está preparada los alumnos que han salido alumnos y alumnas que han salido de esas escuelas

profesionales en este momento han recibido una formación adecuada me dice que los alumnos no entienden por qué están

sin datos en los que sustentarse desde luego me parece muy grave porque sí está usted generando confusión en todas esas personas cuando desde el año mil novecientos ochenta y dos llevamos dando

más que adecuada bien preparados y bien formados por tanto no entiendo cuál es el problema si hasta ahora lo hemos hecho bien y vamos a continuar haciéndolo

no lo entiendo de verdad y por último me habla usted y no quiero ahondar más se va a seguir haciendo desde luego y la cercanía no es desde luego

para que se haga bien evidentemente pero no me dirá usted

porque así se ha hecho durante muchos años y se ha conseguido una buena formación insisto parafinalizar me habla usted de ticks nacionalistas es que ya lo siento pero es que yo pertenezco a un partido nacionalista y sino quizá pertenecería al suyo

desde luego una base nacionalista lógicamente pero eso no impide que las cosas se hagan bien y las cosas se han estado haciendo bien y se seguirán haciendo bien eskerrik asko eskerrik asko

buenos días señor consejero euskadi como sabe usted presenta la tasa junto con navarra más baja

en el empleo de colectivos con discapacidad con mayores dificultades de inserción según el artículo cuarenta y dos de la ley trece barra mil novecientos ochenta y dos conocida como la lismi aunque no fuera más que por el título habría ya que ir pensando en cambiarla

cuyo objetivo principal sea el de realizar un trabajo productivo participando regularmente en las operaciones de mercado y teniendo como finalidad el asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores minusválidos a la vez

a su vez estas entidades de integración laboral y social que son los centros especiales de empleo se desarrollan reglamentariamente en el real decreto dos mil doscientos setenta y tres barra ochenta y cinco de cuatro de diciembre

dice la calificación e inscripción en el registro de centros especiales de empleo

la personalidad del titular justificar mediante un estudio económico la viabilidad del proyecto de empresa estar constituido por trabajadores

y la previsión del personal técnico con las titulaciones necesarias

en nuestra interpelación el real decreto mil cuatrocientos cuarenta y uno barra dos mil diez sobre traspaso

a la comunidad autónoma del país vasco en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo el empleo y la formación profesional para el empleo que realiza el servicio público de empleo estatal establece en su

que en materia de fomento y apoyo al empleo se traspasan todas las funciones de ejecución en materia de fomento y apoyo al empleo y aquellas que en relación con los programas de políticas activas de empleo establecidos en la legislación laboral

en particular y en relación con la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad

desde aquella fecha desde el cinco de noviembre de dos mil diez

ya gobernando también nosotros pero yo le ruego que no utilice el comodín de por qué no lo hicimos nosotros cuando gobernábamos las semanas pasadas debatíamos

sobre lanbide y otras cuestiones asociadas y usted sabe que los centros especiales de empleo contribuyen de un modo importante a la inserción laboral de personas con discapacidad

y por eso traemos esta cuestión aquí hoy por la importancia que tienen porque se han formulado ya consultas seguramente usted conoce y

de un registro de centros especiales de empleo impide desde esa fecha ya tres años que puedan

en lanbide que es donde tendrían que hacerse y por eso le hacemos la pregunta no por qué no se ha hecho hasta ahora sino cuándo cree que podrá hacerse

instándole en este momento también a que en fin ese horizonte sea lo más inmediato posible porque sí hay una demanda para

y tener la habilitación que ello supone por todo eso es por lo que le formulamos la interpelación y nada más por el momento señor consejero muchas gracias por su respuesta

egun on guztioi señor itxaso para responderle quizá de la manera más clara a su interpelación

estamos trabajando hemos iniciado los trabajos para crear ese

pero esos trabajos se encuentran en una fase inicial por lo tanto no voy a poder precisarle quizás con el necesario dándole una fecha cierta sobre cuándo estará disponible máxime teniendo en cuenta que nos gustaría regular más aspectos relacionados con el empleo de personas con discapacidad que importante en sí pero limitado a la calificación y el registro creemos que habría que aprovechar para dar una regulación más amplia a otros aspectos relacionados con el empleo con discapacidad nos gustaría y lo vamos a intentar que sea dentro del próximo año en el dos mil catorce pensamos contar

que sea lo antes posible teniendo en cuenta la complejidad de los procedimientos administrativos de esta naturaleza no obstante lo hemos incluido entre nuestras prioridades

una previsión legal aún a día de hoy incumplida y aunque tampoco es una demanda urgente por parte del sector tuvieron ustedes ocasión de comprobarlo en la reciente comparecencia del ehlabe en este parlamento

que hay varias organizaciones que desean registrarse como centro especial de empleo en estos momentos que nosotros conozcamos hay presentadas ocho solicitudes de calificación como centros especiales de empleo cuatro solicitudes en bizkaia una en gipuzkoa y tres en araba

de la legislación anterior hasta la transferencia de la materia

algunas de ellas no cumplirían los requisitos como bien sabe hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil diez fecha

de las políticas activas a lanbide la solicitud de cualificación como centro especial de empleo se presentaba ante cada una de las direcciones provinciales

una vez presentada la solicitud previa elaboración de un informe técnico que comprobaba básicamente el cumplimiento de los requisitos

barra mil novecientos ochenta y cinco regulador de los centros especiales de empleo

en la que concedía o denegaba el reconocimiento solicitado el real decreto dos mil doscientos setenta y tres barra mil novecientos ochenta y cinco de cuatro de diciembre de centros especiales de empleo

se había detectado que la política de integración de las personas con discapacidad debía pasar de lo meramente existencial a la integración laboral

requiriendo la regulación de la materia este decreto con el reconocimiento como centro especial de empleo permitía acceder también

actualidad evidentemente las solicitudes se presentan para la actividad desarrollada en el ámbito del territorio histórico para el que la entidad estaba acreditada hoy nosotros entendemos que

debemos dotarnos de un marco jurídico de carácter integral en el tratamiento de todos los aspectos relativos al apoyo del empleo en el ámbito de la discapacidad

creemos que el modelo vasco que integra no solamente los centros especiales de empleo sin una especificidad propia como son

incluso el empleo ordinario con apoyos es un modelo ejemplar es un modelo específico y es un modelo que funciona y requiere quizás un marco legal adecuado con fecha uno de enero del dos mil once

pero como usted misma ha reconocido no se creó entonces el marco administrativo necesario para la calificación y el registro de los centros especiales de empleo

que no llegó más allá a la llegada al gobierno nos encontramos por lo tanto con una propuesta que estaba a nivel de borrador las propias entidades del sector pensaban o consideraban que debiera ser modificada en algunos aspectos nosotros mismos iniciamos una evaluación que esperamos completar con diversos estudios

a ese efecto para en la medida de lo posible dar con la mejor regulación para el sector nuestra intención actual es estudiar la posibilidad

un marco legal propio un decreto que como decía antes no solo aborde la cuestión de la calificación de los centros especiales de empleo sino que contemple la cuestión del empleo de las personas con discapacidad en su conjunto que aborde también el mantenimiento de puestos en centros especiales de empleo las unidades de apoyo el empleo en empresa ordinaria la fórmula de convocatorias de ayudas anuales o la regulación de empresas con ánimo de lucro que aspiran a articularse como centros especiales de empleo en este sentido hay experiencias como la de aragón que

donde estas empresas las empresas con ánimo de lucro han de ir de la mano de una entidad sin ánimo de lucro para acceder a ese registro de centro especial de empleo también hay que evaluar la oportunidad o no de establecer un procedimiento único de calificación para todo euskadi

entre otras cosas revisar en algunos casos las calificaciones existentes que quisieran ampliar su ámbito territorial hasta ese momento

provinciales tenían cada uno de ellos un procedimiento y el procedimiento no era homogéneo en los tres territorios son temas que como ve requieren

de un profundo estudio tanto en lo jurídico como también en lo económico son muchas las cuestiones que hay que contemplar y la producción legislativa

y requiere tiempo como he dicho hemos iniciado los trabajos previos hemos abordado la elaboración de un primer estudio para la creación de ese marco administrativo

especialmente con ehlabe que es la asociación que agrupa a siete entidades

de los tres territorios de euskadi agrupando a más de cien centros de trabajo nuestra intención es acometer cuanto antes la revisión y el desarrollo de la normativa en materia de discapacidad

han sido otras la prioridad ha sido poder sacar adelante todos los programas y subvenciones pendientes del ejercicio

y las correspondientes a este año al dos mil trece en las diversas reuniones que hemos mantenido con el conjunto de entidades que representan

era también esa la de intentar que el año dos mil trece al ser un año de transición de un gobierno a otro la máquina no se parara y

lo antes posible para que los centros especiales de empleo pudieran funcionar y no se generaran como

gastos financieros que no ayudaban en nada a las entidades y que servían en todo caso para enriquecer al sector bancario y que tenía muy poco impacto en el ámbito de las personas con discapacidad

permítame una broma señor consejero cuando ha empezado diciendo eso de estamos trabajando en ello me he acordado de algún dirigente que también dijo eso con el acento de tom y jerry

estamos trabajando en ello no dudo no dudo que estén trabajando en ello sin embargo claro usted

tiene que ver con la ejecución de la legislación laboral no estoy planteando y habla de la complejidad yo dispongo aquí

los registros para calificar los centros especiales de empleo son de acceso muy fácil y solamente

no parece que un decreto del consejo de gobierno a propuesta suya pueda tener tantas dificultades

emblemática de referencia que como pocas representa todo lo que son los centros especiales de empleo en euskadi pero estas ya están registradas ya están habilitadas ya llevan a cabo su actividad ordinaria

de lo que nosotros hoy estamos instando estamos hablando de todas aquellas iniciativas

porque el gobierno está trabajando en ello no dudamos que así será

usted tampoco sitúa un horizonte temporal lo cual entiendo perfectamente porque eso evita en todo caso en fin

o quedar en un compromiso ulterior que igual no se puede cumplir pero claro

no ahora se trata de crear ese registro para que las entidades tampoco sé

a día de hoy cumplirían o no cumplirían las condiciones no se trata aquí de evaluar si estarán en condiciones o no ese registro es el que tendrá que dirimir si efectivamente cumplen o no las condiciones que se rigen para ello que de todas maneras están como he dicho en un primer momento recogidas en la lismi y en el reglamento que lo desarrolla por lo tanto

mayor obstáculo que algunos de los solicitantes no cumplan en un primer momento esas condiciones pues eso pasa muchas veces con las solicitudes a la administración

las anomalías y busca la forma de homologar sus credenciales para que efectivamente obtenga la habilitación yo le planteado esa cuestión en el ámbito de lo que son políticas de empleo ámbito de lo que son las necesidades de acción política para favorecer en todo momento acciones que posibiliten inserción empleo y habiendo iniciativas sociales que son capaces de traducirse en creación de empleo porque ya vienen experimentando y vienen teniendo ya en fin algunos periodos de ensayos que les permiten pensar en traducirse en centros especiales de empleo estas cosas que plantea el gobierno

no digo que no tengan razón de ser pero en todo caso constituyen

infranqueable para los que ya querían tener en este momento para el próximo ejercicio una habilitación para poder operar

instarle al gobierno en los próximos días a que esto lo haga

breves esa es la razón por la que nosotros hemos hecho esta interpelación que habrá otros aspectos interesantes que podrán tratarse y que podrán sí

de tareas y de contrataciones a las empresas a los centros especiales de empleo a las personas con discapacidad no se está cumpliendo sería interesante que en esa búsqueda

se encuentren los modos las maneras las garantías adecuadas para que efectivamente esas previsiones normativas puedan cumplirse en favor de los discapacitados

y créese ese registro para que las solicitantes que están digamos en espera puedan formalizar y puedan operar de forma inmediata nada más y muchas gracias

dice usted que le produce risa el hecho de que le digamos que estamos trabajando lo entiendo lo entiendo porque ser capaz de exigir a alguien

no se ha realizado y además decirle que no se utilice ese argumento y decir que el hecho de que se ha estado trabajando produce risa pues

valórelo usted mismo de todas formas seguimos y vamos a seguir trabajando no tenga ninguna duda le pido disculpas por haber utilizado

el decreto no es actividad legislativa sí actividad normativa intentaré ser más exacto con el lenguaje la próxima vez se nos habla de iniciativas sociales ojalá

yo apuesto por ese modelo yo apuesto por ese modelo pero usted sabe igual que yo que para los centros especiales de empleo

aquellos que incluyan a las empresas con ánimo de lucro y aquellos que no incluyan a las empresas con ánimo de lucro y le he puesto un ejemplo

estudiamos la normativa comparada y le he puesto un ejemplo de cuál es un modelo que a mí personalmente me parece digno de estudio

donde las empresas con ánimo de lucro que quieran inscribirse tienen que ir de la mano de una entidad asociativa de una entidad

a finales del mes de diciembre del dos mil doce había temas pendientes de resolver como por otra parte es normal no quiero incidir en ello y fue necesario priorizar

la primera tarea fue acometer el cierre del presupuesto del dos mil doce con la gestión y tramitación de numerosos compromisos de gasto adoptados pero pendientes de gestión solo así era posible

en concreto en relación a los salarios de los centros especiales de empleo a las subvenciones en definitiva para que pudieran funcionar la situación era la siguiente en febrero del dos mil trece en bizkaia se había pagado la nómina de octubre en febrero del dos mil trece

en gipuzkoa también se había pagado la nómina de octubre en álava se había pagado la nómina de agosto completa y la nómina de noviembre a cinco centros perdón

además de pagar todo lo retrasado insisto para no generar gastos financieros

permitir que incurrieran este tipo de entidades

es decir en este momento está pagada la nómina completa del mes de octubre en los tres territorios y hemos resuelto gran número de las presentadas en el mes de noviembre

al mismo tiempo se hizo imprescindible proceder a recopilar la información necesaria para la elaboración de los presupuestos en aquel momento cuya propuesta finalmente como usted sabe no fue aprobada

es ha sido en todo este tiempo el intentar que otras prestaciones también importantes de lanbide pudieran funcionar de la mejor manera

en todo caso tienen mi compromiso lo vamos a hacer este año lo vamos a hacer este año pero yo quiero quedarme con la parte inicial de su intervención euskadi está a la cabeza de la inserción de las personas

aunque es baja treinta puntos por debajo de la de la población en general está en las posiciones líderes del estado

de las personas con discapacidad activas aquellas que buscan o que tienen empleo el veintidós por ciento

en nuestra comunidad fíjese que esta cifra es inferior a muchas de las tasas de paro de diversas comunidades autónomas del estado en la población no en la población con discapacidad y si atendemos al colectivo con discapacidad intelectual su tasa de paro baja al dieciocho por ciento convirtiéndose así

zurea da hitza muchas gracias señora presidenta y sí señor consejero vamos a seguir hablando
de economía social esta pregunta también entronca con la anterior de alguna manera también

políticas de economía solidaria del tercer sector y

es concreto redes para la inclusión social de euskadi

a cinco redes de entidades de acción social de euskadi que trabajan en el ámbito de la inclusión social son muy conocidas

entidades muy conocidas el objetivo descrito en sus documentos es promover una

a través del impulso de políticas y valores basados en la equidad en la solidaridad la participación algunas de esas asociaciones son referentes en la economía social y solidaria

son referentes en estas cuestiones un dato significativo con anterioridad a las elecciones autonómicas vascas de dos mil doce estas asociaciones

redactó un documento de cincuenta y siete propuestas en las que el gobierno vasco el sistema público vasco era

al objeto de realizar peticiones y propuestas de actuación de diversa índole en materia de inclusión social ha tenido algunos protagonismos en algunos ámbitos sobre todo más territoriales que autonómicos bueno hablaban de un nuevo modelo social

como interesante de ese documento que estas asociaciones estas entidades han realizado

que se pueden desarrollar o se pueden ampliar ese colectivo nosotros sí que entendemos que es importante

pues lo valore y en el marco de actuación y del desarrollo de la economía social y desde la responsabilidad que ustedes tienen de inclusión social

la posición la valoración del gobierno vasco en relación con esta cuestión

estamos hablando de reflexiones y de propuestas del gobierno muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko aburto jaunak dauka hitza

bai eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok egun on berriro señor barrio efectivamente conozco a la ekain prácticamente desde su constitución y a las entidades que forman parte de la misma

por lo tanto entiendo que es un documento de máximos un desiderátum ante ese hecho electoral

tampoco creo que exclusivamente el destinatario

fuera el propio gobierno vasco creo que va más allá creo que va al conjunto de las administraciones vascas creo que va al conjunto de los partidos políticos y que aborda cuestiones que superan a este ejecutivo y diría algo más creo que es un documento cuyo destinatario es la propia sociedad en su conjunto en cualquier caso las redes plantea en sus peticiones en cuatro apartados un nuevo modelo social necesario

una prioridad concretada en protección social para una mayor cohesión social una economía al servicio de las personas y un tercer sector reconocido y fortalecido yo creo que las redes cumpliendo con su obligación se mueven entre lo posible y lo utópico y desde ese punto de vista se me plantean muchos puntos de concordancia con ellas la gran mayoría

me he manifestado en múltiples ocasiones nada más muchas gracias eskerrik asko aburto jauna jarraian barrio jaunak dauka hitza

sí efectivamente pues el gobierno sí manifiesta su compromiso pero sí que es cierto y desde luego los partidos políticos también está bien claro

y nosotros hemos recogido desde luego nos hemos sentido aludidos también por el documento pero las instancias fundamentales más de veinte instancias que hay en el documento están dirigidas al gobierno vasco fundamentalmente a las políticas de su departamento en esas instancias también hay

sociales también al servicio de empleo lanbide y luego también hay

incluso municipales está bien claro que la cuestión es esa

de diálogo civil no sé que reflexiones en ese sentido se hace

autonómico de seguir esa línea que parece que hemos visto reflejada en la diputación foral de bizkaia en relación con esas cuestiones que entroncan precisamente con las reflexiones que pide

en sus reflexiones en sus propuestas yo creo que ese es el elemento fundamental luego está el gran elemento que es la propuesta cuarenta y dos donde

encuadradas en el sector de la economía social economía solidaria y tercer sector
entendemos que eso también sigue siendo una referencia importante de la que entendemos que el gobierno se tiene que sentir aludido muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko

esté funcionando entre otras cosas porque dicho con toda humildad pero la

yo mismo la mesa de diálogo civil también funciona en el gobierno vasco

el día dieciocho tenemos la siguiente reunión de la mesa de diálogo civil del gobierno el diálogo con el tercer sector para nosotros es algo fundamental queremos

voy a dar unas pinceladas en el plano de la utopía

creo que de verdad habrá pocas discrepancias en el plano de la contingencia del gobierno para entendernos creo que muchas de las peticiones están incorporadas a nuestro discurso y le voy a poner algún ejemplo

que viven en nuestra comunidad el presupuesto del año dos mil catorce correspondiente a educación salud y empleo y políticas sociales supone la mayor parte del presupuesto total del gobierno se dice en otro apartado protección social para una mayor cohesión social tenemos los niveles de cohesión social más altos del estado comparables a los mejores de europa

de políticas sociales y de políticas de inclusión social es urgente se dice desarrollar el sistema vasco de servicios sociales suscribimos la afirmación

arrastramos una situación no deseada al disponer de una buena ley de servicios sociales aprobada en su caso pero sin memoria económica y nuestro compromiso es

del valor del tercer sector solo decirle que nos hemos comprometido a traer a este parlamento un proyecto de ley del tercer sector que ya estamos trabajando en la mesa de diálogo civil y finalmente decirle que compartimos tanto incluso

que tuve el honor de incorporar a mi equipo de trabajo a quien entonces era presidente de una de esas redes

zurea da hitza bueno en esta cuestión sí que no va a poder usar el comodín de por qué no lo hicimos

esta pregunta que viene a continuación se la planteábamos allá por septiembre no hace tanto pero en realidad pasan muchas cosas en este tiempo y recogíamos manifestaciones que hacía el señor consejero en las que se comprometía mediar entre agentes económicos y sociales tras la pérdida de vigencia de muchos convenios colectivos

y también recogíamos la impresión de que si el conflicto se instala en las empresas será este el peor escenario para la recuperación la conflictividad parece que ha aumentado

ya me entienden que estoy un poco espeso pero lo que queremos saber ha habido varios debates sobre esta materia y este parlamentario ha participado en ellos

que no hay muchas posibilidades de mediar

cómo han quedado cuál ha sido en todo caso el resultado de las mismas y qué han dicho cada uno de los agentes para que esto esté como está a día de hoy

imposibilidad a nuestro modo de ver evidente

de reunir una mesa de diálogo social con esa formalidad con un mínimo de contenido de peso fundamentalmente por la situación en la que se encuentra

optamos por mantener una intensa agenda de reuniones de carácter bilateral como ya le he comentado en diversas ocasiones en este sentido hemos mantenido nueve reuniones en un año con comisiones obreras desde el ocho de enero hasta el cinco de diciembre nueve reuniones

desde el diez de enero hasta el siete de octubre nueve reuniones con ela desde el quince de enero hasta el dieciocho de noviembre

desde el diecisiete de enero hasta el quince de octubre una reunión con uso

dieciocho con confebask además de varias reuniones

de las patronales territoriales entre el siete de enero y el veintiséis de noviembre y dieciocho también con el consejo de relaciones laborales

y con la participación en órganos de encuentro previstos en lanbide en osalan y en hobetuz y en los diferentes conflictos en los que ha mediado el departamento

diversas empresas del país además al objeto de poner encima de la mesa de los agentes una propuesta concreta que facilitara el acuerdo se conformó

como usted ya conoce un grupo de expertos de diversas sensibilidades

elaboró un documento que se trasladó a los diferentes agentes sociales este documento trata los principales aspectos a nuestro entender relativos a la negociación colectiva

que los propios expertos entendían que podían ser asumidos por las partes y elaboramos por eso una propuesta de acuerdo interprofesional que como usted sabe
no llegó a buen puerto eskerrik asko

pero cuál es el estado de cosas porque verá nosotros contemplamos esto de la siguiente manera aquí hay una estrategia sindical clarísima de confrontación que es legítima porque está dentro de lo que es el derecho de libertad sindical y para nada vamos a cuestionar eso

a día de hoy dan unos resultados nefastos para euskadi

usted ha dicho en esta tribuna en alguna ocasión que había centrales sindicales más posibilistas más

de entendimiento porque estamos hablando de negociación colectiva ya sé que lo de la mesa

no es esa la cuestión lo que sí entendemos es que el diálogo social es

a proteger y a fomentar y cuyos resultados suelen ser generalmente muy positivos en cambio lo que vemos es que el gobierno se reúne sí faltaría más tiene contactos

pero a día de hoy la estrategia sindical de confrontación sale triunfante porque

al menos en otros ámbitos posibilidades de acuerdos les voy a recordar siete mil empleos

para parados que no cobraban desempleo o aquellos perceptores de la rgi que fue un acuerdo que se tomó

mostrarse receptivas a la posibilidad de algo

todas estas esfuerzos que ustedes hacen no parece que lleven a término alguno sino que lo que dan como resultado es que toda esa estrategia de confrontación está resultando triunfante

e impidiendo que por mor de su representatividad nada se pueda hacer sin su concurso

y que trate de impulsar acuerdos entre las partes sociales y económicas

en razón de la negociación colectiva que es de lo que estábamos hablando le pediremos

del que ha hecho referencia que han remitido a las centrales sindicales ese

bai mahaiburu andrea señor itxaso quizá conviene

es el que nos encontramos una falta de acuerdo una falta de encuentro la mayor parte de los convenios colectivos bloqueados la mesa de diálogo social como usted mismo ha reconocido

de la mayoría sindical las posturas de la patronal y de las mayorías sindical absolutamente alejadas en el mes de julio la entrada en vigor de la reforma laboral un clima laboral pésimo abundantes conflictos laborales estrategias de enfrentamiento

he apostado por la colaboración he apostado por el acuerdo y efectivamente creo que la estrategia del enfrentamiento no lleva a ningún resultado pero no nos podemos engañar señor itxaso

hoy día muchas de las cosas que antes se hacían en la mesa de diálogo social se realizan en los órganos

en lanbide con la presencia de comisiones obreras de ugt y de la patronal confebask

para aprobar el plan estratégico de lanbide último acuerdo último fruto y se llegan a acuerdos en lanbide todos los meses para poner en marcha políticas activas de empleo que favorezcan la empleabilidad y en mantenimiento de los empleos y ahí nos vamos a segur empeñando con quien quiera participar en lanbide

con quien quiera preocuparse por el empleo en este país eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hamazazpigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen